el gobierno español ha redactado una estrategia logística presentada en diciembre de ese mismo año y estamos todavía a la espera de la plasmación gráfica de esa estrategia en lo que han venido a denominar como mapa logístico es decir falta la territorialización concreta de esa estrategia

representa una innegable oportunidad de futuro tenemos una estratégica ubicación geográfica hemos realizado una apuesta histórica por

poseemos un tejido económico y una cultura empresarial de primer orden es decir contamos con el conjunto de piezas necesarias para afrontar adecuadamente un sector que puede y debe gozar de carácter estratégico con el ánimo de ordenar ese cúmulo de ventajas competitivas ciertas que tenemos

para el desarrollo de la logística y el transporte en euskadi mediante la optimización de los recursos en infraestructuras plataformas y redes de transportes que poseemos el gobierno vasco

la definición de políticas de transporte sostenible la planificación y el desarrollo de la red de plataformas logísticas e intermodales de euskadi como eslabón clave entre la península y europa

eficiente basada en las infraestructuras logísticas y de transporte y actuar en base a criterios de viabilidad económica y autosuficiencia financiera horrenbestez

a colaborar en la elaboración del mapa logístico español de manera leal y diligente como lo hacemos en todos aquellos ámbitos en los que compartimos intereses nuestra apuesta es clara la conexión con europa debe ser clave prioritaria es el concepto sobre el que pivota nuestra acción negociadora máxime si atendemos a la definición de corredores europeos incluidos en la

y fija el marco europeo para su financiación confiamos en que nuestras propuestas sean atendidas la especial situación de euskadi en el eje comunicación península ibérica norte de europa

y verse reflejada en el definitivo mapa logístico cuya definición les compete por esa razón por la existencia de diferentes protocolos de colaboración entre ambas administraciones instamos en concreto al ministerio a articular la participación del gobierno vasco en la definición de la estrategia

ejecutar las conexiones ferro portuarias pendientes apoyar decididamente el aeropuerto de foronda como elemento esencial de carga aérea y finalmente desarrollar todas las plataformas logísticas que nos conciernen esto es pasaia irún

harremanak hobetzeko edo aldatzeko lana egitea la próxima semana mi presencia se limitará al acto institucional que tendrá lugar en las cortes generales

de los eventos o de los fastos preparados para la coronación

y celebramos mucho más porque atendiendo al respeto plurinacional que tiene el monarca

de no sé que último estamento de no sé que último destacamento militar de un régimen absolutamente caduco y obsoleto en cualquier caso nosotros le instamos le pedimos

a algún monárquico irrespetuoso le pedimos que no asista que no participe en esta farsa porque no es

una farsa es una parte de un proceso necesario para dejar las cosas atadas y bien atadas como hizo el anterior borbón

y esta segunda transición que hoy nos quieren trasladar necesita de todos estos procesos de todos estos pasos para seguir dejando amarrada cerrada con un candado de siete llaves la voluntad de los pueblos la voluntad de

y de los derechos ciudadanos y ciudadanas porque nada hay más anacrónico nada hay más antidemocrático que mantener una sucesión dinástica

que dar la palabra a los ciudadanos que dar la palabra a las personas es profundamente antidemocrática la institución es en definitiva la imagen más de una crisis de régimen de una crisis de régimen de un régimen que se basa y se sustenta en principios absolutamente anacrónicos y medievales nosotros ya sabemos que no acude a título personal ni siquiera en representación de su partido si así fuera nada tendríamos que objetar en esta cámara sería en todo caso parte

nos gusta verle como lehendakari de los vascos de las tres provincias que se agrupan en la comunidad autónoma vasca y en esa consideración en el respeto a la mayoría social de este pueblo su lugar precisamente no está en el congreso de los diputados honrando la coronación de un nuevo borbón sino con los ciudadanos y ciudadanas que se oponen que parece que somos y le incluyo mayoría

modelos de estado basados en la sucesión dinástica existen fórmulas más democráticas como la republicana u otra en nuestro caso la república vasca no nos obliga el protocolo a asistir a cualquier proclamación entendemos no nos obligaría a asistir a la recepción de cualquier sátrapa de cualquier lugar del mundo no nos obligaría

para seguir decorando este lifting tóxico con el que nos quieren someter a todos y a todas y aunque usted quiera darle una consideración especial a su presencia la realidad que van a trasladar al mundo es que acude como súbdito

por tanto le pedimos que no acuda y que lo haga por respeto a la mayoría social y política de la comunidad autónoma vasca porque va como lehendakari insistimos que lo haga por respeto a la democracia porque participar de ceremonias que no van en el sentido democrático de la igualdad es ir

con todos los pueblos que pretenden y quieren liberarse y por todos los ciudadanos y ciudadanas que aspiran a regirse por parámetros más democráticos hay que
elegir nuevamente o en la calle o bunquerizados con el poder eskerrik asko matute jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

y desde el respeto institucional y aplicamos la cortesía y el respeto en relación a una decisión política para la que no hemos sido consultados ni tenidos en cuenta

ni partidarios se trata de la toma de posesión de un jefe de estado y mi presencia querrá significar también la necesidad de un nuevo modelo de estado plantearé mi presencia institucional en madrid con un carácter crítico constructivo

y mientras haya la mínima oportunidad de diálogo y de acuerdo y a ello ayude el respeto institucional merece la pena explorarlo cuando no la haya entonces hablaremos de otras cosas nosotros llevamos treinta y cinco años aprovechando

trabajando por avanzar desde el acuerdo para defender el autogobierno de euskadi y su desarrollo no ha sido fácil

pero hemos logrado avanzar y lo seguiremos logrando con respeto y con responsabilidad sin participar en celebraciones que no compartimos matute jauna

las radios del ente público de radio televisión vasco radio euskadi veinticuatro horas y eusko irratia y radio vitoria durante dos horas culminando

por un conflicto laboral insólito aunque dirijo la pregunta a la señora consejera de cultura permítame señor lehendakari que traslade al conflicto laboral abierto en e i te be

diálogo negociación acuerdo y ratificación justo lo contrario de lo que está haciendo la dirección general de e i te be

para intentar salir de esta crisis y tanto usted como sus consejeros reprochan creo que acertadamente la falta de responsabilidad de quienes no quieren sentarse en la mesa de negociación lo que está ocurriendo en eusko irratia es la antítesis de lo que ustedes pregonan se ha convocado una oferta pública de empleo que en realidad supone un ere

la responsabilidad es de la directora general de su equipo de dirección y de quienes han permitido que se lleve a cabo esta convocatoria partido nacionalista vasco eh bildu y el sindicato lab la dirección de e i te be

nosotros dimos nuestra confianza a la persona que propuso el gobierno vasco y se la retiramos porque no ha sido capaz de ajustar un proyecto coherente con su cometido

en la gestión de recursos humanos por eso señora consejera le preguntamos su opinión sobre las decisiones la directora general que afectan a los recursos humanos sin acordarlo con los representantes legales de los trabajadores

al margen por tanto de todos los principios en los que dice sustentar el lehendakari su acción de gobierno muchas gracias

por tanto señor unzalu debo contradecir su afirmación de que la dirección de e i te be no ha trabajado este proceso en el ámbito natural en el que se resuelven los asuntos referidos al personal es más le diré que además de haberse trabajado donde correspondía

a fin de que esta garantice el cumplimiento de los citados principios legales no obstante es cierto que el número de plazas ofertadas ha sido considerado por este órgano social insuficiente

entienden y respetan esta postura pero al mismo tiempo comprenden que el alcance del empleo público ofertado mediante dicha convocatoria se ha realizado atendiendo a las necesidades organizativas previstas

en aras a afianzar la sostenibilidad presente y futura de la sociedad eskerrik asko uriarte andrea unzalu jauna zurea da hitza

pero en cualquier caso usted nos ha relatado parte de lo que ha ocurrido porque la conclusión es que no se ha conseguido el acuerdo con la mayoría social de

por las medidas que se proponen y por la ope que se propone usted en más de una ocasión ha reconocido errores en la gestión de esa dirección general lo cual le honra sí

colocado en la página web de e i te be un enlace para

en cualquier caso lo que nosotros le venimos a decir es que sabiendo que hay dudas legales sabiendo que hay setenta y nueve trabajadores que van a ser despedidos sin garantías de recuperar la plaza que los tribunales les han reconocido sabiendo que se recortan sí o sí treinta plazas

sabiendo que ni siquiera están definidos los destinos de las plazas en la convocatoria de la oferta pública de empleo como aparecía patente

sabiendo que tiene una mayoría sindical en eusko irratia en contra sabiendo que habrá recursos judiciales que dejarán todo el proceso en el limbo si sabiendo todo esto usted

será usted y su gobierno le pedimos una vez más lo que piden los trabajadores y nosotros hemos trasladado a todos los lugares

definan qué radio televisión quieren con qué recursos cuentan y cómo adaptar los recursos a las nuevas necesidades empiecen la casa por los cimientos y no por el tejado

es responsabilidad de este gobierno tomar las decisiones que correspondan y la primera debe ser parar
este despropósito muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko

antes de tomar ninguna decisión se han llevado acabo todos los análisis necesarios que han sido recogidos en la memoria de la convocatoria pública de empleo

como consecuencia del cual se han alcanzado acuerdos en dos de los tres puntos clave de la negociación y finalmente la dirección general ha llevado acabo el asunto al consejo de administración como usted bien sabe ya que la iniciativa ha recibido el apoyo favorable del setenta por ciento de sus miembros

esfuerzo en busca de consenso con la representación social a fin de ofrecer la mejora de las soluciones diálogo negociación y acuerdo eskerrik asko uriarte andrea

lehendakari jueves veintinueve de mayo esta cámara con los votos del partido nacionalista vasco y bildu volvía a proclamar que euskal herria tiene derecho a la autodeterminación

usted lehendakari enviaba el siguiente mensaje hay que cerrar más pronto que tarde un acuerdo con el estado según se explicaba para evitar que bildu lidere el soberanismo

sobre qué bases la independencia muchas gracias eskerrik asko

gu guztion esku dago irizpide hauei bide politikoa irekitzea ustedes señora quiroga forman parte de la ponencia de autogobierno que todos los grupos de esta cámara han creado para presentar las propuestas debatirlas y acordarlas confío en que el trabajo de esta ponencia se sustancie

que sea ratificada por la sociedad vasca y respetada

el gobierno reitera la disposición a contribuir al acuerdo para un nuevo estatus político eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

gracias señora presidenta yo creo lehendakari que a estas alturas

que no es novedosa sino como usted ha dicho es una trayectoria de ya hace más de treinta años que es crear el problema ser el problema y luego jugar

y esto usted sabe que daña euskadi y daña la legitimidad institucional esa que usted representa como lehendakari el partido nacionalista vasco puede jugar con su estrategia partidista pero yo creo que no puede jugar no debe jugar

y por eso creo que es necesario definir posiciones creo que es necesario decir claramente a los vascos qué ofrecemos cada uno y cuál es el modelo para el país vasco cuál es ese modelo que ofrecemos para la sociedad vasca del siglo veintiuno mire yo

porque tengo un compromiso con el desarrollo y el crecimiento de esta tierra como tantos otros vascos que tienen ese mismo compromiso con euskadi y no son ni del partido nacionalista vasco ni de bildu porque la vasquidad señor lehendakari se mide por el compromiso por el compromiso de cada uno de nosotros y no por la ideología

ustedes la independencia señor lehendakari es el modelo que defiende su partido y bildu pero ni es el modelo de euskadi ni es el modelo tampoco de todos los vascos es el suyo

y eso debe defenderlo y debe explicarlo creo que es su obligación y creo que se lo merecen todos los vascos saber a qué atenerse y eso no es poner

sea precisamente eso poner este país patas arriba nuestra sociedad se merece que no le sigan mareando con nuevos pactos sencillamente porque no es posible superar hoy el consenso y la transversalidad y el alcance de dos grandes pactos que sí están ahora vigentes que son el constitucional la soberanía de los tres territorios históricos a través de la disposición adicional y el acuerdo estatutario que otorga el mayor nivel competencial de todas las regiones europeas y ustedes lo saben lehendakari otra cosa es que avancemos que mejoremos que busquemos ese máximo nivel competencial

explotando sentimientos que no le pertenecen en exclusividad hasta hace poco su modelo era québec o flandes ahora parece que ya no sirven ahora son cataluña y escocia en definitiva lehendakari lo que creo es que el gobierno no quiere definirse quiere alargar el culebrón y jugar a un victimismo que creo sinceramente ya no

porque siempre llega alguien que deja de lado esas ambigüedades y con todas su radicalidad lo supera lehendakari creo que es el momento de poner encima de la mesa dos modelos diferenciados el de quienes quieren romper y el de quienes queremos caminar juntos y le pregunto lehendakari cuál es su modelo para euskadi

o ir por separado el de ser más o el de ser menos muchas gracias eskerrik asko quiroga andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

habla usted del problema ha hablado de la vasquidad de la independencia del caminar juntos qué ofrecemos cada uno mire ha hablado también de escocia de flandes

ni estados unidos ni suiza ni flandes ni escocia ni cataluña euskadi y habla usted del problema y le voy a decir que resolver un problema comienza por reconocerlo no imputarlo a quien no lo ha creado como usted lo está haciendo reconozca usted el problema

usted inició su andadura reconociendo la necesidad de un nuevo liderazgo en el partido popular vasco habló de favorecer el cumplimiento del estatuto habló de un nuevo modelo de estado de la necesidad de adecuar su política

habló entonces y volvió a hablar tras las elecciones europeas habla usted señora quiroga pero qué hace

no responde a los emplazamientos no presenta usted un proyecto para euskadi usted habla y no hace pero deja hacer deja hacer

ustedes no han demostrado la más mínima voluntad de cumplirlo la actitud del estado español es de recentralización

y se siente cómoda preguntando yo le responderé cuantas veces sea necesario

el desarrollo de la ponencia de autogobierno donde usted tiene que presentar su propio proyecto para este país y si lo que en el fondo usted busca son excusas en declaraciones de lehendakari para abandonar la ponencia de autogobierno

señora quiroga usted conoce la realidad vasca conoce la necesidad de actualizar el autogobierno de garantizar la bilateralidad efectiva conoce la demanda generalizada arraigada para constitucionalizar el derecho a decidir y vive la oportunidad

asuma su responsabilidad aplique su liderazgo en el partido popular en este nuevo tiempo para propiciar un acuerdo político que cierre definitivamente el contencioso vasco sea valiente lleve sus planteamientos a la ponencia

plantee sus respuestas la sociedad vasca está esperando escucharlas europako kide gara partekatutako burujabetza duen erkidego bateko kide

gracias presidenta buenos días a todas y a todos señores consejeros señor lehendakari señor consejero el pasado día seis el sindicato de enfermería denunció la saturación del servicio de urgencias del hospital vitoriano

ciento veintiocho pacientes tuvieron que ser atendidos en los pasillos

y medios necesarios y adecuados a lo que se suma de personal de enfermería usted rápidamente contestó diciendo que esto era radicalmente falso esta situación concreta sin embargo es solamente una muestra más de las consecuencias de los recortes que en materia sanitaria están aplicando tanto el gobierno de españa como el gobierno vasco y que están afectando

lo que no se puede decir señor consejero es que los recortes que impulsa el gobierno de españa sí

y sin embargo los recortes que impulsa el gobierno vasco en el uso de sus competencias no afectan a los ciudadanos vascos esto es lo que no se puede decir y por lo tanto tendrán que asumir ustedes que sus recortes también afectan al conjunto de los ciudadanos se ha ampliado la jornada laboral no se cubren muchas bajas y permisos la contratación temporal se imponen cambios de servicios a los profesionales se ha suspendido la carrera profesional para ahorrar entre otras medidas y obviamente todo esto afecta a la calidad del servicio de

en las últimas décadas sin embargo esto está cambiando y está cambiando como digo consecuencia de los recortes que el gobierno de españa pero también de los recortes que ha impulsado y recortes presupuestarios que ha venido impulsando este gobierno por todo ello le pregunto cómo están afectando los recortes a la calidad del servicio que presta

a partir de ahora para dar la vuelta a esta situación reconocen este problema o lo niegan gracias eskerrik asko maneiro jauna

lehendakari jauna egun on guztioi señor maneiro el gobierno vasco está invirtiendo este año dos mil catorce por cada ciudadano vasco

en salud en la situación económica y con los presupuestos públicos que usted conoce

somos la comunidad autónoma que más dinero destina a la salud además la apuesta de este gobierno por las políticas sociales

por el sistema sanitario público es incuestionable si no viaje usted un poquito desde el inicio de esta legislatura el lehendakari urkullu transmitió que este gobierno no gastaría lo que no tiene y efectivamente hay inversiones que nos hubiera gustado hacer

nos afecta a todos incluso a los que no somos responsables de la misma no le afecta a usted por que a mí y a la ciudadanía general sí pero mire

y lo digo con modestia creo que lo estamos consiguiendo se ha alargado la jornada laboral de los trabajadores de la administración pública estamos trabajando

si se incrementa la jornada laboral para trabajar lo mismo disminuye las horas de contratación temporal pero el gobierno está comprometido con el empleo público

en su plantilla estructural no ha disminuido ni va a disminuir ninguna de ellas

y dos médicos porque no estamos escatimando en recursos donde se necesitan y también lo diré el gobierno vasco y el sistema sanitario de euskadi no puede aislarse

la situación que viven las personas las empresas y el conjunto de la sociedad no sería responsable

se verá recompensado en el caso del sistema sanitario gracias a ese esfuerzo estamos manteniendo el sistema y su calidad porque osakidetza sigue siendo un sistema sanitario y de calidad el gobierno va a seguir manteniendo

de su plantilla estructural y permítame recordárselo somos la mayor empresa de euskadi una empresa pública la que mayor empleo da a mujeres un motivo más de orgullo y vamos a seguir esforzándonos porque siga así y la calidad del servicio

a diario no puede ser de otra manera siempre ha sido así y se lo agradecemos

que hace mucho que no ha ido usted a sus urgencias si es que ha ido alguna vez

no se atiende a pacientes en los pasillos no es verdad lo tiene usted muy fácil de comprobar hoy mismo si quiere y sepa también que la cobertura de enfermedades del servicio de urgencias del hua

son adecuación a la situación de crisis económica y a la realidad presupuestaria esto es así asuma la responsabilidad y reconozca que ha habido recortes y que por lo tanto atienda también a la evolución que ha sufrido osakidetza en los últimos tiempos estamos mejor que antes estamos igual

estamos claramente peor usted habitualmente se compara con el resto de comunidades autónomas sí podemos estar mejor que algunas de ellas pero estamos peor que antes

cuando les interesa se comparan o miran europa miren también lo que están haciendo países europeos ha habido recortes o no ha habido recortes sí ha habido y recortes y lo han denunciado los sindicatos efectivamente el secretario

ha caído porque la jornada se ampliado y no se cubren bajas y señalaba que en este momento están trabajando

que hace unos años va a haber movilizaciones o no va a haber movilizaciones usted no las observa o qué es todo mentira las denuncias son falsas se ha aumentado la jornada laboral se han eliminado puestos de trabajo

está la situación de los profesionales que enferman la privatización de servicios las no sustituciones las centrales sindicales hablan de humillación

por lo tanto atienda a la evolución estamos peor que antes o estamos mejor

señor lehendakari hace unos meses conocimos ya que

fondos públicos a medios afines la iniciativa de otro grupo de esta cámara destapó abundante contratación publicitaria que su gobierno señor urkullu directamente beneficiaba

deia diario de noticias de álava diario de noticias de gipuzkoa onda vasca que con contratos sui generis contratos ad hoc por importes

euros en contrataciones al margen de las contrataciones de campañas generales de publicidad curioso

las que son abiertas a los demás medios en libre concurrencia

beneficiaban las que se hicieron a ese mismo grupo de noticias resulta que este se beneficiaba de campañas específicas así nos enteramos que bajo manga mediante un sistema de contratación

a estos medios afines excluyen a otros que cuentan con mayor difusión en euskadi un claro trato de favor a medios

que nos parece denunciable y poco ético pero es que además la justificación de esas adjudicaciones entrarían en muchos casos señor lehendakari

por la ley de publicidad institucional en concreto además de confirmar que el gobierno del pnv usa fondos públicos para beneficiar a la prensa afín

hemos tenido constancia de algo todavía más grave que lo han hecho además con el ánimo de controlar la información de manipular los contenidos

a finales de dos mil trece a medios del grupo noticias más de veinte mil euros para incluir en sus páginas informaciones

la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa

que supone un auténtico escándalo claro así ustedes pretendían extender

para efectivamente tratar de ocultar de tapar la voz de quienes podíamos defenderla nunca desde luego desde

esa ley el gobierno pagaba para que esas opiniones se insertaran como información como reportaje informativo de los propios medios ocultando que se trataba de publicidad encubierta del gobierno vasco

de que fuera aprobada definitivamente la ley orgánica en las cortes generales

su recurso ante el tribunal constitucional suponemos que para caldear el ambiente estos hechos dicen muy poco desde luego de esos medios de comunicación del deia del grupo noticias de álava de gipuzkoa

grupos afines al pnv dicen poco de ellos los que cobran por hablar mal del gobierno de pp

aparecen un poco solo como los aprovechateguis de esto pero aquí el responsable es el gobierno del pnv el responsable es en concreto el departamento de educación señora consejera pero

el responsable máximo es usted señor urkullu publicidad pagada

con personajes contrarios a la reforma educativa que estoy convencido

aquellas personas que fueron utilizadas por esos medios de comunicación para cargar contra la lomce ni siquiera sabían

conscientes de que estaban siendo utilizados en un reportaje pagado por el gobierno

con el título miedo control ideológico y esperanza

y de programas informativos en la radio el subtítulo los presentaba como agentes educativos y sociales que consideran que

lo hacían previo pago del gobierno el segundo subtítulo

confían en que el plan heziberri dos mil veinte presentado por el ejecutivo de urkullu sea el mejor antídoto contra la ley wert esto decían

a partir de ahí comenzaban una serie de perlas tan baratas que

objetivo supuestamente fácil de manipular pero lo mejor es el preámbulo lo mejor de esta información pagada por el gobierno vasco es el preámbulo

además lo hacían como aclaración al contenido excusa no pedida decían los tres medios escritos que justificaban la publicación de la citada mesa redonda asegurando que lo hacen

hacemos esto prestando nuestras páginas al debate y la reflexión en torno

la emisión correspondiente al citado contrato consistió en cinco entrevistas consecutivas a representantes y asociaciones vascas navarras y catalanas

para qué se van a andar con tonterías en onda vasca al fin al cabo usted

les pagaba para hacer lo que hicieron ahora yo creo que lo que corresponde es que salga usted aquí

porque lo que le he dicho yo aquí lo que les he relatado aquí son datos aportados por el propio gobierno

nos cuenta un cuento nos cuenta una película si quiere pero señor lehendakari es muy grave lo que ha ocurrido es muy grave y nos gustaría saber si van a seguir pagando con recursos públicos a medios afines para que

como contenidos informativos para manipular a la opinión pública en contra del gobierno de españa nos gustaría desde luego saber si tiene usted la intención de rectificar si va a exigir responsabilidades y desde luego esperamos

lehendakari señor oyarzabal esta interpelación me da la oportunidad de poder explicar este hecho porque va a comprobar que lo ocurrido queda muy lejos de la interpretación realizada por usted con interés de descontextualizar y retorcer la realidad

permítame por lo tanto iniciar mi respuesta rechazando ese enfoque rechazando totalmente

ha habido un evidente interés en desubicar determinadas actuaciones con el objetivo de incomodar al departamento y por extensión al gobierno

al acuerdo con unos medios de comunicación para que abordaran a través de una mesa de debate un asunto tan importante y de calado social

la aprobación de la citada ley parece bastante evidente que durante su tramitación durante los meses en los que hemos venido abordando esta iniciativa legislativa del gobierno de españa ha tenido un importante eco social no solo aquí en euskadi

también aquí en la comunidad autónoma de euskadi tampoco voy a extenderme en recordar cuál es la posición del gobierno vasco al respecto como bien saben la de un rechazo frontal más allá del recurso de inconstitucionalidad y de las posibles medidas jurídicas

invasión competencial un rechazo ante una ley injusta que pretende solucionar o disimular sus problemas a costa de frenar la evolución de quienes avanzan con paso firme

creo que no hay demasiadas dudas con respecto a lo que pensamos un claro rechazo a la ley que es el mismo rechazo que genera en la comunidad educativa

a la hora de seguir analizando esta cuestión tenemos claro que la posición de este gobierno no necesita de publicidad pagada para defender su postura más aún

y hacía tiempo que habíamos anunciado nuestra decisión de recurrirla al tribunal constitucional así pues de qué oposición al gobierno de españa me está hablando

y nuestras intenciones ya adelantadas por qué decidimos impulsar una mesa redonda un debate en torno a esa nueva ley de educación esa sí es nuestra opinión una pregunta más lógica y que nos va a servir para simplificar este asunto

porque consideramos que sería interesante más allá de conocer opiniones sueltas entorno a esa ley

y generar un debate sereno llevar a cabo un debate sosegado entorno a las consecuencias que su aplicación tendrá en el sistema educativo vasco

en las opiniones del resto y que como consecuencia ofrezcan al lector una herramienta para su reflexión particular siempre es bueno contrastar opiniones ese era nuestro objetivo algo que considero es fácil de entender jakina hona helduta

ez da iragarkirik azaltzen con el objetivo de intentar aclarar de qué estamos hablando le voy a trasladar todos los detalles

y no es un cuento como acabo de señalar los diarios que forman parte del grupo noticias realizan a mi departamento una propuesta de inserción publicitaria

dicho acuerdo recoge una serie de inserciones en determinadas fechas hablamos por tanto de publicidad departamental muchas inserciones se llevarían acabo antes de la finalización de dos mil trece

la radio onda vasca nos traslada una propuesta para la puesta en marcha

la propuesta viene acompañada de un justificativo cuyo extracto paso a leer para que se entienda mejor lo que se perseguía con esa iniciativa la propuesta decía así

ley orgánica para la mejora de la calidad educativa ha generado y sigue generando debate oposición e incluso rechazo

dada la importancia que tiene la educación desde onda vasca proponemos hablar de ello sacar del debate de la esfera política y llevarlo al ámbito más técnico posible acercarlo a la sociedad proponemos realizar una mesa redonda

un espacio con reconocidos especialistas en el ámbito jurídico educativo profesional para plantear la cuestión desde el punto de vista de la afección real a la sociedad y a su futuro

ese era el texto que acompañaba la propuesta beraz ekimena onartu genuen hain zuzen ere ekimenaren xedea

muchas gracias señora presidenta yo desde luego lamento que

salir aquí a dar explicaciones sobre un hecho de enorme gravedad aunque

contratar una mesa de debate pero qué debate señora consejera si todos pensaban lo mismo

solo a los que están en contra ninguna voz ninguna voz que discrepe qué debate es ese dicen que su rechazo a la lomce en frontal hasta el punto de saltarse la ley

que están dispuestos a pagar a sobornar a medios de comunicación o a chutar a los amigos para que más de la lomce pero esto es una respuesta adecuada de un gobierno

de contrastar opiniones yo creo que nos está tomando el pelo además lo triste es que usted tiene la cobardía de venir aquí encima a responsabilizar a los medios prácticamente viene a decir que es que

proponer algo que ustedes no podían rechazar pero ustedes no tienen una radio y una televisión pública

debates serios sobre una reforma educativa tienen que pagar a medios privados afines

yo creo que no se sostiene su explicación pero mire le voy a leer y aprovechando que está el lehendakari

se trata de la ley de publicidad y comunicación institucional de euskadi que yo creo que ustedes tienen la obligación de cumplir yo no sé si se la han leído señora consejera empieza así el principio básico y fundamental que debe regir la comunicación de las instituciones públicas con la ciudadanía

pero le voy a leer un artículo el artículo tres definición de las campañas institucionales campaña institucional de publicidad es toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje objetivo

eso es publicidad institucional artículo cinco prohibiciones de la ley señora consejera señor lehendakari prohibiciones expresas

no se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad o de comunicación

legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias eso no se puede hacer desde otra institución con publicidad pagada y menos encubierta

señora consejera no se podrán difundir campañas institucionales de publicidad que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la administración o entidad promotora o contratante y yo le recuerdo que en esos reportajes ni aparecía qué era publicidad y muchísimo menos qué era publicidad pagada del gobierno vasco mire se trata de publicidad encubierta con esto que le he leído se trata de prevaricación

es incumplimiento de artículos de una ley aprobada por este parlamento que usted tiene la obligación de cumplir y tiene la obligación aquí

a quienes tomaron esa decisión y si fue usted quien tomó esa decisión es usted la última responsable y a la que le exigimos

esto es un hecho grave usted está tratando de manipular

qué crédito pueden tener ahora esos medios cada vez que hablen de cualquier cuestión

pagando la información se trata en mi opinión de un uso inadecuado del dinero público pero es que es un incumplimiento flagrante de la ley se favorece a medios afines se favorece a medios afines supone un fraude menoscabo un menosprecio absoluto al papel que juegan también los medios de comunicación en mi opinión un abuso de poder

desde luego en opinión del grupo popular muy poco democrática un intento de engañar a la sociedad y desde luego de utilizar métodos absolutamente reprochables
que nos parece una vergüenza que se utilicen en estos tiempos hoy por un gobierno democrático nada más muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

señor oyarzabal yo creo que no escucharme primero porque estaba convencido de que le iba a contar un cuento y le he dicho que no era un cuento otra cosa es que a veces la verdad no nos interesa porque nos interesa más desprestigiar

otra cosa es que se genera un debate se propone un debate

para decir cuál es la postura del gobierno yo le he explicado exactamente cómo ha sido

extraída y según cómo sacada de prensa por supuesto que llega al final a una información totalmente deformada

yo sigo pensando señor oyarzabal que impulsar fomentar un debate reflexionar sobre un tema es bueno en sí mismo

sobre todo teniendo en cuenta el interés que ha generado porque supone un cambio de las reglas del juego supone un cambio muy importante para el sistema educativo es un interés realmente el de la sociedad en tener un debate y eso es lo que nosotros hemos querido propiciar porque nuestra postura

por todas las vías establecidas lo hemos dicho claramente no necesitábamos pagar publicidad

de comunicación que participaron en la organización de los debates actuaron con absoluta libertad

en ningún momento ni de la venta de una iniciativa del departamento sino de una labor periodística que contaba con el impulso del departamento eso sí

el departamento de educación política lingüística y cultura mantiene relación con distintos medios de comunicación son muchos los medios con los que hemos trabajado

no puede decir que estamos pagando unos medios en concreto es decir es muy fácil

qué es lo que han pagado a estos medios porque todos los contratos son públicos pero en la pregunta parlamentaria figuraba concretamente a esos medios es decir

a propósito se extrae a qué medios se pregunta vale porque ustedes no han preguntado a ver qué ha pasado con el resto de los medios esa es la explicación de por qué esos medios tampoco le convence por supuesto claro

pero yo creo sinceramente aquí hay una propuesta por parte de unos medios

se cambia el contrato en contenidos y se establece un debate porque nos parece mucho más interesante eso es lo que ha ocurrido

esta digamos que no es una interpelación novedosa le hemos planteado la misma cuestión en varias ocasiones la última vez que le planteamos esta cuestión pues fue hace y es muy probable que en próximas fechas sigamos insistiendo sobre la cuestión porque lo cierto es que no podemos obligarle a usted a que deje de ser nacionalista pero sí creo que tenemos la obligación como representantes

estamos en la obligación de exigirle al lehendakari que concrete qué es exactamente lo que quiere para euskadi

qué pasos va a dar para ello con quién los va a dar y qué plazos el propio lehendakari plantea por lo tanto ya digo que no vamos a tratar de convencerle a usted de que esto de ser nacionalista es algo muy reaccionario

no vamos a convencerle a usted de que esto de levantar fronteras y apostar por la división es prácticamente incompatible con el mundo globalizado actual

en que usted debe explicar en este parlamento cuál es el proyecto que el gobierno y el lehendakari

va a dar para tratar de alcanzarlo y si va a respetar la legalidad vigente o si piensa saltársela conoce expresamente cuál es la legalidad vigente si la entiende y si entiende efectivamente que puede cambiarse pero que debe cambiarse a través de los procedimientos legales establecidos recientemente votó el derecho a la autodeterminación con eh bildu

que aparcáramos el derecho a decidir ahora lo enarbola

que no es tal habla de nuevo estatus político acaba de hacerlo hace unos minutos habla de nación vasca en europa habla de actualización del gobierno del autogobierno dentro de los marcos legales establecidos pero sin saber cuál es

y cuál es su propósito último habla también de reforma constitucional pero

de que usted desconoce cuál es el procedimiento establecido para modificar la constitución es decir creo que usted no reconoce está en clara minoría para llevar adelante una reforma constitucional habla también de modernización del sistema institucional actual

recientemente miembros destacados del partido nacionalista vasco participaron en la cadena humana en favor del inexistente derecho a decidir y también han hablado recientemente de un nuevo pacto es decir no sabemos exactamente qué es lo que el partido nacionalista vasco quiere no sabemos qué es exactamente lo que el lehendakari quiere o quizás sí lo sepamos pero en todo caso

usted qué futuro quiere para euskadi qué modelo de estado defiende en qué modelo de estado se sentiría cómodo el partido nacionalista vasco

si en un estado federal asimétrico confederal si directamente lo que quiere es la independencia si pretende romper el país si estamos ya

etcétera en definitiva que nos lo aclare que nos aclare cuál es su proyecto que abandone la ambigüedad y la cobardía que les caracteriza que explique su proyecto nosotros si quiere usted en la réplica le explicamos cuál es el nuestro porque he escuchado que le exigía a la señora quiroga que el partido popular debe presentar cuál es su modelo cuál es su proyecto nosotros podemos presentar el nuestro pero queremos que usted explique el suyo

atencion por favor esto es una emergencia abandonen el edificio por las salidas